tengo el honor de comparecer ante el pleno de este parlamento para dar cuenta del informe ordinario de la institución del ararteko del año dos mil doce

en dicha intervención realicé un análisis cuantitativo de las quejas que durante el pasado año nos ha presentado la ciudadanía expuse sintéticamente las actividades realizadas por la institución

y puse de manifiesto el grado de cumplimiento del deber de colaborar con el ararteko de las administraciones públicas

reguladora del ararteko denomina valoración general de la situación de protección de los derechos en la comunidad autónoma

sobre el nivel de protección de derechos en todas y cada una de las veintiocho áreas de trabajo más oficina de la infancia y la adolescencia

a subrayar los aspectos más relevantes de la valoración que nos merecen desde el crisma de una salvaguarda óptima de los derechos de las personas

poniéndole énfasis en los colectivos más vulnerables desde el punto de vista de la protección de los derechos

el pasado año en términos globales las actuaciones relacionadas con la atención a la ciudadanía y el control de las administraciones públicas

cuantificados durante el pasado año quejas de atención personalizada de nuestras tres oficinas consultas telefónicas y actuaciones de oficio

del año dos mil once lo que determina un incremento de un cuarenta y dos coma seis por ciento en número de atenciones en nuestras tres oficinas de vitoria gasteiz bilbao y donostia san sebastián

lo cual muestra la importancia creciente del servicio de información y asesoramiento

canalizando las reclamaciones ciudadanas a través de los expedientes de queja cuando

a la instancia resolutoria competente o dando asistencia jurídica necesaria para enfocar adecuadamente la solución del problema

hemos mantenido ochenta y nueve reuniones con organizaciones sociales cincuenta y cinco con diferentes administraciones públicas

el pasado año tras evaluar la actuación de la administración objeto de la queja

la administración afectada ha corregido y modificado la actuación que originó la reclamación en el ochenta y cinco coma setenta y ocho por ciento de los supuestos el pasado año hemos de constatar de nuevo de lo cual nos congratulamos enormemente la ausencia de actividad criminal por parte de eta tras su anuncio público en octubre de dos mil diez

ni coaccionadas ni extorsionadas es una excelente noticia para los derechos humanos

su disolución incondicional desde nuestra posición de defensa de los derechos humanos a todos nos corresponde hacer el máximo esfuerzo por reforzar las circunstancias que nos conduzcan inexorablemente al final del horror que hemos padecido en las últimas décadas para alumbrar un nuevo tiempo histórico en euskadi basado sin excepciones en la ética el respeto y protección

así como en el cumplimiento íntegro de los derechos de las víctimas de los grupos terroristas

derechos recogidos y regulados en la ley vasca cuatro barra dos mil ocho no han sido todavía dotados íntegramente del contenido previsto en la ley ni implementados en todas su plenitud lo cual constituye una doble exigencia legal y ética

que el año dos mil doce ha sido un año en el que la violencia machista ha arrebatado la vida a dos mujeres en euskadi caridad de los ángeles rodríguez arrieta en tolosa y tere burrola en asparrena esta lacra que sigue amenazando a tantas mujeres nos ha enfrentado en estas últimas semanas a tres asesinatos brutales en las personas de amagoia elezkano

ninguna sociedad que se denomine civilizada puede permanecer incólume y ajena a esta violencia que nos conmueve debiendo activar todos los recursos de los que disponemos con el objeto de detenerla hablaré de la oficina de la infancia y la adolescencia expondré seguidamente las cuestiones más significativas de esta oficina que opera como todos ustedes saben

el trabajo de dicha oficina se ha traducido desde una perspectiva cuantitativa en trescientos trece expedientes de quejas tramitados trece de ellos de oficio

la consideración final del estado de los derechos de niños y niñas no obstante se han tenido en cuenta además las

y presentadas por familias en las que en un alto porcentaje existen menores este dato junto a la realidad abordada en el estudio citado nos lleva a la primera conclusión a destacar del informe alertar del impacto que la crisis está teniendo en un número cada vez más importante de niños niñas y adolescentes las carencias materiales posicionan a la infancia a una situación de desventaja y vulnerabilidad futura

pueden afectar a su desarrollo educativo social y laboral por ello resulta clave tener en cuenta a la infancia en la toma de decisiones ante los retos

voy a referirme en estos momentos a la convivencia escolar exclusivamente ya que el resto de las cuestiones serán presentadas a lo largo de las quejas relacionadas en el área de educación

con el maltrato entre iguales insistimos en que se deben evitar actuaciones burocratizadas y en que se debe

del maltrato proporcionar apoyo y protección a las víctimas y mantener una buena comunicación con las familias afectadas en el ámbito de los servicios sociales para la infancia en desprotección es necesario extremar la atención a las familias con niños y niñas en los servicios sociales municipales

insistimos una vez más en el especial cuidado a los procesos de emancipación que en el caso de los menores extranjeros no acompañados deberán tener presenta además cuestiones administrativas y de documentación de especial relevancia para su futuro

y tampoco con un protocolo de actuación de los servicios de vigilancia y seguridad de los centros residenciales de menores en desprotección

ineludible ya una reflexión a fondo del papel de este personal en los centros y su consecuente ubicación intervención y control continuamos reclamando avances en el diagnóstico y reconocimiento de los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género en abolición de barreras formales o administrativas para familias monoparentales así como en la coordinación y colaboración entre los puntos de encuentro familiar y los juzgados derivantes

así como un desarrollo incipiente del plan de acción de la estrategia de enfermedades raras en euskadi

especialmente urgente nos parece la respuesta a las personas con trastornos de personalidad en un alto porcentaje adolescentes y jóvenes debemos así mismo prestar atención a los trastornos de conducta

a españa relativa a someter a examen el fenómeno de la sobreprescripción de la medicación

la red de centros y programas socio educativos del sistema de justicia juvenil parece mantener el dimensionamiento adecuado para satisfacer las necesidades y decisiones de los juzgados hay no obstante

un mayor uso de la conciliación y de forma más global una justicia más amigable y cercano a niños niñas y adolescentes donde sus derechos

a ver protegida su intimidad y privacidad se vean siempre garantizados

el trabajo de campo realizado en euskadi en el marco del proyecto europeo rainbow ha puesto de manifiesto una carencia notable del sistema educativo para integrar visibilizar y promover el pleno respeto a los derechos a la diversidad afectivo sexual y de género por último queremos hacer un nuevo llamamiento a reforzar y extender la conciencia social sobre los derechos

su opinión y a recibir y dar información por ello

que garanticen la participación de las personas menores de edad en los diferentes ámbitos de afección a sus días educación

la reiteración de quejas sobre el proceso de admisión del alumnado hace que un año más siga vigente en nuestra opinión la recomendación que desde esta institución venimos planteando a la administración educativa para que extreme el cuidado en la gestión de este proceso con la aplicación cabal de los criterios prioritarios previstos para los supuestos de insuficiencias de plazas y revisando o reconsiderando la aplicación de aquellos otros que

en esta ocasión queremos poner el acento también en que cuando sean las comisiones territoriales las que efectúen las propuestas de escolarización

permitan sostener como se afirma el acceso universal del conjunto de la población a todos los centros docentes de enseñanza no universitaria máxime en estos momentos en los que algunas familias se dificultades económicas para hacerse cargo de los gastos de escolarización que algunas de las propuestas planteadas en general

de todos modos las mayores dificultades siguen produciéndose en la etapa inicial de cero a tres años sobre todo en la oferta de aulas de dos años la actual coyuntura de crisis económica ha traído como consecuencia una mayor demanda de enseñanzas de idiomas y formación profesional

a que trate de apurar todas las posibilidades que permitan incrementar la actual oferta y posibilitar así

y una formación de idiomas que hagan más fácil la incorporación de nuestros jóvenes al mercado laboral reiteramos también una vez más la necesidad de agilizar la respuesta a las necesidades sanitarias especiales durante el horario escolar sanidad y el derecho a la salud

el pasado año nos han mostrado algunas de las consecuencias de la nueva configuración legal

ya que de lo contrario el derecho a un tratamiento íntegro puede quedar afectado afortunadamente la suspensión del real decreto ley dieciséis barra dos mil doce de veinte de abril

al igual que en años anteriores hemos considerado fundamentadas las quejas que han superado el tiempo de espera estándar

destacamos el esfuerzo que se está realizando desde el departamento de sanidad por transformar el sistema sanitario con la finalidad de adaptarlo a las necesidades de las personas con enfermedad crónica

la estrategia de clonicidad planteada por nuestra administración sanitaria pretende situar al paciente en el centro del sistema

fomentar el conocimiento de su dolencia y aportar herramientas para el autocuidado

aplicación de protocolos de actuación formación de profesionales y participación de pacientes sin embargo con relación a las personas afectadas en sensibilidad química múltiple y electro hipersensibilidad no percibimos ninguna mejora

los avances han sido notables en los últimos años se registra una insuficiencia o falta de apoyo institucional en las estructuras intermedias de rehabilitación en el ámbito de salud mental hospitales centros de día

y recursos de rehabilitación psicosocial algo que venimos señalando en los últimos años

con la consiguiente implicación de los niveles autonómico foral y municipal

la crisis económica y social que atravesamos se produce en un aumento de las dificultades de los hogares para hacer frente a sus obligaciones y gastos habituales las situaciones de paro de precariedad de descenso notable de los ingresos de incertidumbre de riesgo de pobreza que viven cada vez más familias en euskadi muchas de ellas pertenecientes a la clase media

ante este estado de cosas el estado social debe desplegar todo su potencial para que los principios de inclusión y cohesión sociales en los que se fundamenta

queden debidamente salvaguardados para todas las personas que residen en euskadi

aún así las tasas de pobreza y precariedad real del pasado año no alcanza los niveles de mil novecientos ochenta y seis y mil novecientos noventa y seis en gran medida gracias al impacto positivo del sistema de prestaciones renta garantía de ingresos

por esto mismo el sistema vasco de garantía de ingresos como factor de cohesión social y de protección social requiere ser dotado de los medios e instrumentos necesarios para hacer frente a la labor tan importante de

no en vano la mayoría de las mil diez quejas gestionadas en el área de inclusión social del ararteko se refiere al funcionamiento de lanbide

las dificultades para presentar la solicitud los retrasos excesivos en la resolución de las solicitudes o las suspensiones de las prestaciones aplicando procedimientos y formas no garantistas no han sido de recibo

debemos conseguir que sea un sistema ágil en cuanto el plazo de resolución

para ello tanto los recursos materiales en particular las aplicaciones informáticas como los recursos humanos de todas y cada una de las oficinas de lanbide debe ser suficiente y adecuados garantizando la eficiencia del servicio que se presta

asimismo están teniendo problemas importantes de financiación lo que hace peligrar su continuidad la función que se desarrollan es muy necesaria para nuestra sociedad porque ofrece cercanía y flexibilidad a la ciudadanía

los requisitos que establecen las mismas por lo que estas entidades cubren un espacio humanitario que en otro caso nadie atendería el apoyo a su labor es fundamental para la cohesión social y en la lucha contra las desigualdades

son requisitos humanitarios mínimos que no deben eludirse en razón de los recortes sociales

en la que aumenta las dificultades de las personas más vulnerables jarraian euskaraz

urtean honako izenburuko lanari prestakuntza bultzatu zen aplicación de los derechos de las personas usuarias y consumidoras de la comunidad autónoma del país vasco

especialmente este año en el que sin incremento de la plantilla hemos absorbido con un compromiso modélico

sin detrimento de su calidad los tiempos de respuesta ni de la buena opinión que las personas que acuden a nuestra institución ponen de manifiesto ello ha sido posible además de por el compromiso y el trabajo extra de los trabajadores

por las reformas internas en la organización y funcionamiento y por la incorporación de aplicaciones avanzadas en el sistema informático todo lo cual

recientemente la defensa de la dignidad de la persona del derecho a una vida digna de todas las personas que viven en euskadi y de todos sus derechos en particular en los tiempos que corren los derechos sociales así como

seguirán constituyendo el norte y la razón de ser de nuestro trabajo como corresponde a un defensor del pueblo para poner punto final a mi intervención no me queda sino agradecerles su atención y recabar una vez más su apoyo a este comisionado parlamentario en el cumplimiento adecuado de las funciones estatutarias y legalmente atribuidas

a todas y a todos buenos días señor lehendakari no vamos

concretas sobre el informe del ararteko más allá de agradecer el trabajo realizado

todo su equipo un trabajo realizado en relación a asuntos de gran interés para el conjunto de los ciudadanos en relación

violencia machista la salud la educación la concienciación de la vida laboral y familiar los derechos de los inmigrantes la inclusión social la pobreza la desigualdad y el incremento de esta desigualdad las personas sin hogar la denuncia de la homofobia el derecho a la vivienda los desahucios en fin y un largo

nos detalla el ararteko el número de quejas y los sectores y administraciones a las que se dirigen estas reclamaciones y el éxito obtenido en las mismas

a las de otros años con los aumentos previsibles pero por otro lado muy preocupantes fruto de la preocupante

que estamos sufriendo en esta breve intervención quiero denunciar de nuevo como ya lo hice el año pasado que el ararteko vuelve a abogar otra vez por el acercamiento de los presos de eta y por la excarcelación de los que sufren enfermedades digamos que son

obsesiones históricas del ararteko mientras sigue sin decir una sola palabra

resolver lo hicimos el año pasado y hoy también volvemos a hacerlo queremos denunciar esta obsesión evidente del ararteko por

la excarcelación de los que sufren supuestamente enfermedades insisto mientras no dice absolutamente nada de la necesidad de resolver

de resolución para nosotros esa es la mayor vulneración de los derechos ciudadanos que una víctima de la banda terrorista siga sin saber quién puso la bomba

de su ser querido o que no se haya juzgado y condenado

del ararteko un año más este asunto es obviado por el ararteko algo deberían decir algo deberían escribir en su informe anual sobre esta materia tan sensible pero siguen sin querer hacerlo a pesar de que el año pasado se lo pedimos en esta misma tribuna

de volver a hacerlo el ararteko tiene que exigir el esclarecimiento de los trescientos veintiséis crímenes cometidos por eta pendientes de resolver pedir además a las autoridades competentes que la concesión de cualquier tipo de beneficio penitenciario o incluso la inclusión en cualquier plan de reinserción esté vinculada a la colaboración del preso con la justicia para que se aclaren esos graves delitos y se pueda llegar a conocer sus autores materiales juzgarles y condenarles

de las que tantas veces hablamos hay otro tema en el que quiero incidir es el asunto de los sueldos y el régimen de contratación de los empleados del ararteko

y dos tercios de la plantilla sean cargos de confianza nombrados a dedo a nosotros no nos parece en absoluto y esto habría que cambiarlo urgentemente ya sabemos que la ley prevé que el personal de asesoría lo nombra y lo cesa el defensor de turno para garantizar su independencia y autonomía y que es la norma general en todas las defensorías de españa pero nosotros no estamos de acuerdo con esta forma de actuar y con esa ley los asesores deberían contratarse como el resto de los funcionarios a través de convocatorias públicas en las que se mida el mérito y la capacidad independientemente de quién ocupe el máximo puesto de responsabilidad en este organismo y respecto a los sueldos tenemos que decir e insistir

por eso esperamos con ansiedad esa propuesta que se ha comprometido a presentar el ararteko en el mes de septiembre sobre reducción de sueldos esperaremos

a esa propuesta por otro lado nos llama la atención

se han realizado en euskera únicamente el tres coma cuarenta y siete por ciento de las quejas lo cual evidencia que la exigencia de conocimientos lingüísticos a todos los trabajadores de la administración vasca un exceso y un abuso como nosotros venimos denunciando creo que queda demostrado una vez más únicamente apenas cuatro

con lo cual en fin se evidencia una vez más como decía que la exigencia de conocimientos lingüísticos a todos los trabajadores de la administración vasca solamente puede ser considerado

abuso en fin para terminar nosotros estamos dispuestos a abrir otro debate y es el del propio mantenimiento o no de esta institución autonómica teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos creo que este es otro debate que antes o después debería abrirse y nosotros estamos dispuestos a abrirlo estamos dispuestos

sobre el mantenimiento o no de esta institución autonómica y en todo caso y en todo caso la necesidad de redimensionar profundamente esta

gracias señora presidenta buenos días señorías

ante este pleno de la cámara para presentarnos el informe del año dos mil doce desde el grupo parlamentario popular queremos agradecer y poner en valor

desde su creación en mil novecientos ochenta y nueve y máxime la que han desarrollado en el dos mil doce en este pasado año

porque han tenido un fuerte incremento de trabajo quiero felicitarles a todos los que trabajan en esta institución porque

han tenido un impacto positivo en la sociedad un impacto positivo en las personas que han acudido a esta institución en busca de ayuda y asesoramiento

que reciben estas actuaciones en las encuestas o cuestionarios que se realizan entre las personas atendidas es una evidencia

y es una realidad que hay un aumento de la confianza de la ciudadanía en esta institución y este impacto positivo es el fruto de una constante y eficaz diálogo

por ello queremos reconocer el trabajo serio y riguroso que se realiza desde la institución como garante que es de los derechos de los ciudadanos ante las administraciones

hoy nos ha presentado en el pleno de esta cámara el informe que ya tuvimos la ocasión de conocer el pasado día veintinueve de mayo en la comisión de derechos humanos y esta es una presentación merecida

sino también era necesario tener la oportunidad de realizar un análisis con mayor profundidad este

el ingente trabajo realizado en dos mil doce un año en el que la crisis ya arrecia y por tanto un año en el que aumentaron las necesidades siendo los recursos más limitados las actuaciones relacionadas con la atención a la ciudadanía y el control de las administraciones cuantificadas nos arroja una cifra

un aumento de casi el cuarenta y tres por ciento con respecto al año anterior

porque el análisis no se acaba hoy como tampoco se acaba la necesaria tarea de seguir insistiendo en esa labor de apoyo a los ciudadanos y entrando en el estudio del mismo lo primero a destacar es que al hacer un análisis sobre las quejas nos encontramos con que tras evaluar la actuación de la administración

se ha considerado que existía alguna actuación incorrecta en el cincuenta y cinco por ciento de las quejas analizadas

ha corregido y ha modificado la actuación que originó la reclamación en casi el ochenta y seis por ciento de los supuestos por otro lado también es importante y necesario que la opinión pública en general tenga conocimiento de las administraciones que han colaborado

su colaboración y cómo no conozca aquellas

dirigirles un apercibimiento analizadas todas las áreas en las que se han presentado quejas

que la mayoría de las quejas recibidas tiene relación con los derechos sociales son sobre todo cuestiones de naturaleza social

casi el noventa por ciento de las quejas están relacionadas con su funcionamiento y sus actuaciones en materia de gestión de las rentas de garantía de ingresos así como de la prestación complementaria de vivienda y es que la gestión ha sido muy deficitaria cuestión que podría ser atribuido como se ha dicho a un aumento de la carga de trabajo por la crisis pero también al hecho

la gestión de ambas ayudas sociales que hasta entonces desarrollaban las diputaciones pero

hay que lamentar que hubo dificultad para hacer las solicitudes varias visitas con los consiguientes retrasos

la violencia de género constatamos que constituye y sigue constituyendo una preocupación central para el ararteko

compartimos que es de una relevancia absolutamente prioritaria la lucha y el esfuerzo dirigido a esa erradicación

contra las mujeres está en la desigualdad estructural

cada vez adquiere más importancia la exigencia a las distintas administraciones de la puesta en marcha de acciones positivas para logra erradicar la violencia contra las mujeres es una tarea de todos en cuanto a las discapacidad desde la institución del ararteko los derechos de las personas con discapacidad han ocupado siempre un lugar importante de su actividad

queremos destacar y valorar muy positivamente por la importancia que tiene el proyecto de mapas colaborativos del ararteko en el informe del dos mil doce se recoge que en dependencia ha habido quejas

y movilidad en el transporte quejas relativas

en las quejas planteadas como consecuencia de la disconformidad con el grado de dependencia reconocido como ya se indicaba en el informe extraordinario sigue habiendo problemas al pretender hacer un análisis cuantitativo fiable en materia de dependencia y promoción de la autonomía personal

el departamento de empleo y asuntos sociales del gobierno vasco la diputación foral de álava la diputación foral de gipuzkoa la diputación foral de bizkaia

en especial resulta preocupante que los datos ofrecidos por la diputación de bizkaia no se corresponde con lo solicitado personas valoradas sino que se refieren a valoraciones

la consecuencia primera es que ello nos impide hacer un análisis de conjunto relativo a la comunidad autónoma del país vasco en cuanto a las personas que se encuentran oficialmente en situación de dependencia el porcentaje que supone de la población vasca así como una comparativa por territorios y llama la atención que todavía persistan estas disfunciones

que tiene en sus manos datos importantes y sobre todo referidos a un sector de la población

como se nos informa sí parece que ya existe una buena receptividad y también voluntad de converger

pero queremos poner también el foco en las tres recomendaciones generales que se realizan la primera la elección del servicio especializado y de hospital en el ámbito del sistema vasco de salud

sean valoradas con flexibilidad y que se compaginen las necesidades de organización sanitaria con las peticiones de las personas usuarias en muchos casos muy fundamentadas la segunda recomendación hace un llamamiento a los ayuntamientos para que modifiquen sus ordenanzas fiscales

cuando este por su naturaleza puede ser aplicado durante varios años durante varios ejercicios fiscales y la tercera recomendación general se dirige al departamento de seguridad del gobierno vasco a osakidetza y a los policías locales

mecanismos de coordinación entre ellas y haya la garantía de que las familias de las víctimas de accidentes sean informadas con la máxima inmediatez posible también destacamos las actuaciones de oficio aquellas en las que el ararteko emprende por iniciativa propia que ya se ha destacado

y en este apartado es prevalente la actividad de la oficina de la infancia y la adolescencia que valoramos muy positivamente y por último y aunque el tiempo es limitado pero la materia lo requiere

después de que a finales del dos mil once la organización terrorista eta anunciase

no hayamos tenido que lamentar ningún asesinato como consecuencia de la actividad terrorista pero es un hecho que la organización terrorista eta sigue ahí y eso supone ya una amenaza por ello a pesar de la indudable mejor situación actual nos preocupa

pero no en el informe no se formulen exigencias de su disolución

de colaborar con la justicia lo recordaba la coordinadora gesto por la paz cuando compareció en la comisión de derechos humanos muchos delitos sin esclarecer trescientos veintiséis delitos queda mucha investigación queda mucho por hacer porque aunque tenemos

leyes que obligan a los poderes públicos a promover el asentamiento de una memoria colectiva porque conviene reiterarlo y recordarlo una vez más que las víctimas del terrorismo son víctimas

para ese concreto ejercicio del derecho a la memoria es necesario que en el ámbito municipal por ser el más cercano a los ciudadanos se realicen se sigan realizando actos de homenaje y reconocimiento a las víctimas del terrorismo esto es el desarrollo del mapa de la memoria crucial iniciativa

a las víctimas del terrorismo del gobierno vasco y es verdad

siempre ha querido manifestar su cercanía a las víctimas del terrorismo y es aún si cabe más verdad que ha mostrado siempre su oposición más radical a todos los actos de violencia terrorista pero sus pasados informes anuales trataban del derecho a la memoria en el ámbito municipal

negativamente reseñable que muchos municipios en los que se han producido atentados terroristas o que cuentan entre sus vecinos con víctimas del terrorismo no hayan considerado necesario adoptar ninguna iniciativa en su memoria la enorme carga simbólica del compromiso de las corporaciones municipales

contribuiría sin duda a propiciar la deslegitimación social y política del terrorismo lo he citado textualmente

en su informe del dos mil diez los municipios en los que se había homenajeado a las victimas

también y si bien se constataba que en el dos mil once

al mapa de la memoria se recogían los datos

los municipios donde se habían realizado homenajes y se reflejaban también los porcentajes de la población que vive en esos municipios que por cierto son altos

pero en el informe del dos mil doce no se reflejan esos datos y lamentamos y echamos en falta que no aparezcan porque sigue siendo necesario un trabajo continuo

de todos porque siguen siendo necesarias medidas activas para la deslegitimación ética social y política del terrorismo porque también sin duda

es la deslegitimación de la violencia quedan muchas cosas por hacer quedan muchas tareas importantes para alcanzar la convivencia para resarcir las heridas originadas en tantos años de violencia y muerte siempre injustificada quedan muchas cosas que hacer

fidedigno y pedagógico de lo ocurrido y todos todos estamos obligados a seguir haciéndolas como usted lo venía haciendo ararteko

un años más el grupo socialista queremos agradecer el trabajo que desarrolla la institución del ararteko

que sienten que no son adecuadamente atendidos por las distintas administraciones en la protección de sus derechos una labor que volvemos a reivindicar porque en estos tiempos de recortes y ajustes

están siendo precisamente los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas y aquellas instituciones que deben velar por los mismos

basado en una sanidad gratuita universal equitativa y de calidad quienes creemos que el acceso a la educación en igualdad de condiciones con independencia de la disponibilidad de renta de la procedencia de cada cual de su religión o ideología es la mejor inversión para una sociedad próspera quienes también abogamos

quienes creemos en todo esto defendemos que exista una institución que vele porque todos los ciudadanos y ciudadanas sean tratados por igual por parte de todas las administraciones por eso mientras en otras comunidades se eliminaba la figura del defensor del pueblo los socialistas

aquí en euskadi la legislatura pasada la defensa de la institución del ararteko a nosotros no nos sobran agentes institucionales que ayudan a corregir los defectos de la gestión diaria y contribuyen a reforzar este modelo social que defendemos

y queremos también agradecer al ararteko y a todo su equipo que haya sabido ser receptivo

en torno a sus presupuestos gastos y estructuras de personal

y en este trámite parlamentario quisiéramos dejar constancia de otras reflexiones para que sean también tenidas en cuenta en el futuro la institución del ararteko tiene como función

de las distintas administraciones que puedan afectar a esos derechos desde esa perspectiva realiza las recomendaciones pertinentes que permitan recoger esas actuaciones o inacciones el periodo de crisis económica que atravesamos ha hecho que se incrementen de forma exponencial

que están relacionadas con los efectos que esa crisis ha tenido está teniendo en nuestra sociedad pasamos de mil seiscientos noventa y seis quejas

a dos mil novecientos cuarenta y tres en dos mil doce esto aparte de la sobrecarga de trabajo para la estructura del ararteko supone que la mayor parte de este incremento se refiera a cuestiones relacionadas con la prestación de servicios que tratan de luchar contra la exclusión social

reproduciendo constantemente todos los años como decía desde dos mil ocho ininterrumpidamente el ararteko se está consolidando como un instrumento útil y recomendable para la resolución

en estos momentos de penuria resulta más necesaria que nunca como decía antes

a medida que se van reconociendo los efectos que en nuestra sociedad están teniendo las políticas neoliberales

más complejas y acuciantes se están haciendo las necesidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas por lo tanto las reclamaciones a la administración estarán por una parte cada vez más relacionadas con asuntos de necesidad primaria pero también por otra con asuntos de mayor complejidad

se hace referencia a la preocupación de la institución por las quejas recibidas

y más recientemente nos hemos encontrado con el caso de las aportaciones subordinadas productos financieros los dos

entre los clientes de los mismos estos y otros asunto acaban judicializados y nosotros

necesarias para no interferir en el funcionamiento del estado de derecho basado en la separación de poderes no estamos pidiendo al ararteko que no actúe que no trate de aportar

queremos prevenir sobre la tentación y de hecho así ha ocurrido que puede darse de que en muchos casos

se emita opinión antes o paralela a la de la justicia este parlamento como cámara de representación de la voluntad popular tiene la obligación de dar audiencia a la ciudadanía

por la propia administración o por otros agentes sociales económicos este parlamento se ha implicado para buscar una solución a las miles de familias afectadas por las aportaciones subordinadas los socialistas estamos convencidos de que vamos a contar con la ayuda experiencia y conocimiento de la institución del ararteko

por otra parte también nos sumamos a la preocupación por la persistencia de la violencia contra las mujeres violencia que como aquí ya se ha dicho anteriormente hunde su raíz en las bases estructurales de nuestra sociedad

la labor del ararteko de todo su equipo y de todo el personal que intenta atender las demandas de los ciudadanos cuando sienten que las demás

salga de aquí o llamo a la seguridad edo getxoko

tenía usted que haber pedido intérprete como la señora china del juicio anterior horrelako adibide asko eta asko daude zoritzarrez oraindik

tenía que haber pedido intérprete como el chino del juicio anterior adibide bi hauek argi uzten dute administratuen hizkuntza eskubideak ez direla behar beste errespetatzen